berriro señor toña me sorprende y además creo que se contradice cuando dice usted que no hay que preguntarse por lo que pueden hacer sino por lo que están haciendo y eso creo que no van a contar

porque nos ha nombrado la rgi nos ha nombrado los planes de empleo

pero luego por otra parte dice usted que admite

entonces si la desigualdad va en aumento si se están creando situaciones nuevas de pobreza

usted cree que con lo que están haciendo es suficiente no efectivamente no

que es una cuestión presupuestaria entendemos seguramente tenemos otro punto de vista en cuanto cómo hay que repartirse y dónde hay que repartirse el dinero de los presupuestos

hay que fortalecer las políticas sociales sin duda también económicamente y para eso hace falta un compromiso presupuestario porque que nos nombre el decreto de cartera y el mapa de servicio sociales

es que eso no nos está aportando nada nuevo que nos diga que existen las ayudas de emergencia social

sabiendo que el año pasado los ayuntamientos ya pusieron diez no nos aporta nada nuevo pero le recuerdo

a modificar ese decreto para llegar a situaciones nuevas eso lo tendrían que empezar a estudiar de alguna manera entendemos que tendrían que empezar a traer propuestas en torno a eso

qué medidas nuevas no qué se está haciendo qué medidas nuevas tienen que proponer porque el sistema de protección

es bueno con sus defectos con sus recortes pero sirve de alguna manera a paliar muchas situaciones de pobreza

a día de hoy la situación ha cambiado y como la situación ha cambiado las medidas también tienen que ser otras nosotros por lo menos lo vemos claro nos habla de los desempleados de los de larga duración pero qué pasa con esas cincuenta mil personas que se quedan fuera

a los servicios sociales por qué no están recibiendo sus derechos esos que por ley les corresponde eta zer gertatzen ari da gure gazteekin

proposamenak ikusi nahi ditugu son las familias las personas las que están padeciendo este calvario no son números no son datos situaciones que también afectan a nuestros mayores que sirven de apoyo

son situaciones que sin duda contribuyen por desgracia a aumentar casos de depresiones problemas psicológicos problemas de salud mala alimentación

gozan de la temperatura adecuada y estoy diciendo todo esto porque no solamente compete a su departamento porque creemos que aquí el gobierno tiene que hacer el esfuerzo en todos los departamentos no solamente en el suyo y

el foco el trabajo tenemos que centrarlo en las personas que no acuden a los servicios sociales y le voy a nombrar la campaña que acaba de presentar la diputación foral de gipuzkoa

que no acceden a las ayudas sociales desde una manera propositiva y positiva esa es una manera también de empezar que creo que no costará mucho dinero voy a terminar con unas palabras del señor ibarretxe que leímos ayer en la prensa y se las traslado a usted es una reflexión una pregunta que decía renovamos nuestro compromiso

hacemos eso o nos dejamos llevar por la marea de la desigualdad

batean elkartzeko estamos en momentos de cambio de ciclo económico

los datos macroeconómicos pero yo soy consciente somos conscientes en el gobierno de que las consecuencias de la crisis perdurarán en el tiempo

que deben ser atendidas por los servicios sociales los datos de empleo marcan con altibajos una tendencia positiva pero menor que la que nos gustaría a todos

yo también tengo un hijo en el paro revertir los efectos de una crisis tan larga y profunda no es fácil y paliarlos exige muchos esfuerzos esta realidad hace que se mantenga tensión sobre los sistemas de protección sobre la renta de garantía de ingresos

sobre la demanda de vivienda social sobre los servicios forales y municipales y en este entorno estamos empeñados en dotar garantizar y defender el sistema de rgi

no hay otro sistema de parangón desde luego en el estado y muy pocos en toda europa

porque los hay todavía que los quieren señalar con el dedo

como si fuesen delincuentes y vagos estamos aumentando cada año la dotación de las ayudas de emergencia social insuficientemente

eficiente y equitativa de recursos escasos se han aprobado un fondo extraordinario para atender situaciones de pobreza energética insuficiente pero algo hemos avanzado

nos hemos comprometido a ello y seguimos empeñados en la mejora de lanbide con las dificultades que tenemos todos lo sabemos

en dotarle de mejores instrumentos de gestión en lamejora de sus procesos en la consolidación de una estructura y una plantilla

a las necesidades de las personas que demandan sus servicios y para finalizar desde el área de empleo este año se van a movilizar

del plan de empleo correspondientes a dos mil quince no nos corresponde a nosotros generar empleo sino generar condiciones para que los empresarios generen ese empleo le recuerdo los datos del año anterior

y casi ciento veinte mil personas que mejoraron su cualificación tengo la hoja siete perdida

yo creo que podemos estar de acuerdo en los diagnósticos lo único que seguramente nos separa son las limitaciones presupuestarias que tenemos y cómo creemos nosotros que tenemos que hacer las reasignaciones presupuestarias y a qué partidas tenemos que dedicar cuánto dinero

una buena formación de los trabajadores a ojos de todo el mundo es la base fundamental de la economía moderna y competitiva pero en un estado de depresión de la economía de tasas de paro inaceptables y precariedad en las condiciones de trabajo favorecida por una reforma laboral salvaje la formación de trabajadores tanto de los desempleados como de los ocupados constituye una de las principales herramientas de los poderes públicos para intentar paliar la situación en primer lugar para conseguir que las personas con trabajo puedan consolidar sus empleos en la escala laboral y en el caso de los parados para que mejoren sus competencias y consigan acceder a empleos dignos y para que tengan mientras no se consiga ese objetivo una actividad y una ocupación en su vida diaria en el caso de la formación para trabajadores ocupados esa tarea la desarrolla en euskadi

una fundación creada en mil novecientos noventa y cinco mediante un acuerdo tripartito entre patronal sindicatos y gobierno vasco

algunas de las cuales las principales son debidas a la inseguridad inicial con la que se movió en su financiación ya que nació de uno de esos pactos presupuestarios que acostumbra a hacer el pnv en madrid

que finalmente abandonaron el patronato en dos mil siete lo cierto es que la financiación de hobetuz

cuando pasó a depender exclusivamente del gobierno vasco con la transferencia de las políticas activas de empleo a las que usted hacía referencia en la interpelación anterior y que su actividad según declaraciones del propio gobierno vasco en muchas ocasiones ha sido claramente positiva para la sociedad vasca porque quien mejor que las empresas los sindicatos

en nuestras estructuras económicas y poner los medios para satisfacerlas adecuadamente pues bien en diciembre pasado el patronato de la fundación hobetuz aprobó y asignó financiación a los distintos programas

para este año dos mil quince han pasado ya casi tres meses de entonces y ni el consejo de administración de lanbide ni el consejo de gobierno

pese a contar con su correspondiente previsión presupuestaria este retraso se produce cuando en españa el gobierno del pp tiene anunciada una reforma en los planes de formación una reforma que conociendo el antecedente de las desregulación laboral del ejecutivo de rajoy y su afición por desguazar los servicio públicos uno tras otro podemos temer que no va a ser precisamente

una reforma que a estas alturas del año y teniendo en cuenta la subsiguiente adaptación normativa dificultaría mucho su aplicación efectiva en el presente ejercicio

el retraso del gobierno de euskadi en ratificar lo que ha diseñado ya

con las intenciones del gobierno de españa al respecto han surgido dudas

le han surgido dudas a los sindicatos y preocupaciones

de esa demora en dar curso a la convocatoria de cursos del dos mil quince porque conocemos por desgracia los precedentes con los que este gobierno

o identitarias sin embargo se acomoda gustosamente en otros terrenos a los dictados del gobierno del pp es decir se esconde bajo las reformas del gobierno central con las que está encantado pero sin decirlo disimula un poco sobre todo cuando esto le supone algún tipo de ahorro

de desatender necesidades sociales de su responsabilidad o de dejar de abordar actuaciones ya presupuestadas y muy convenientes para la ciudadanía y hay muchos ejemplos por eso nuestro grupo ha presentado esta interpelación queremos saber cuáles son las verdaderas razones del retraso en poner en marcha planes de formación muy necesarios para los trabajadores y sobre todo queremos saber las intenciones del gobierno a lo que además de lo expresado como duda se puede poner hoy encima de la mesa la sentencia

millónes de euros supongo que el consejero de empleo y políticas sociales señor toña

y con los sindicatos y habrá tomado el pulso de su departamento y podrá decirnos algo concluyente

porque tiene usted todos los resortes en sus manos los políticos y los presupuestarios cargos de su departamento forman parte del patronato de hobetuz que creo que se reúne este mismo lunes varios de esos altos cargos están en el consejo de administración de lanbide y usted está en el consejo de gobierno órgano al que le corresponde en este caso la última palabra quizás tendría que haber dirigido la pregunta al señor gatzagaetxebarria en vez de a usted para saber cuáles son las verdaderas intenciones

y cuente a los trabajadores y trabajadoras vascas qué pueden esperar este ejercicio en materia de formación ocupacional y cuándo van a poder optar a un curso que mejore su capacitación y competencia si esa es la decisión política que ustedes llevan el lunes

señor pastor para ceñirme rápidamente al fondo de la cuestión y dar respuesta a su interpelación

por otra parte la convocatoria de los programas de este ejercicio no está afectada por los planes que sobre esta materia tiene el gobierno del estado dos afirmaciones importantes

y por supuesto si hay un gobierno vasco que actúa al dictado del gobierno de españa

en concreto hemos interpuesto diez recursos de inconstitucionalidad y tres conflictos positivos de competencias todos ellos sin resolver aún por el alto tribunal

cuestiones que afectan a los programas de activación para el empleo

las protecciones de los trabajadores de tiempo parcial las condiciones básicas de emisión y uso de tarjetas de estacionamiento etcétera todas ellas que afectan precisamente al mundo

es y usted lo sabe señor pastor porque en la legislatura anterior tuvieron que también seguir todos estos procedimientos las convocatorias se elaboran por la comisión de textos de hobetuz fundación colaboradora de lanbide

una vez consensuados los textos que no siempre suelen ser fáciles de las convocatorias se elevan al patronato de la fundación para su aprobación y si esta se produce se envían a lanbide

pero no significa que la competencia sea inmediata porque todavía tenemos más pasos

y para ello tiene que contar con un crédito presupuestario normalmente

como muy pronto en la segunda quincena del mes de enero del año presupuestario pasado tras ese informe de la oficina de control económico se eleva al consejo de administración de lanbide para su aprobación

si la cuantía de la convocatoria supera los cinco millónes ha de ser aprobada además en el consejo de gobierno

luego cuando administrativamente se ha contado con el crédito correspondiente se tramita la convocatoria con el fin de que la oficina de control económico realice su informe preceptivo yo sé que todo esto es muy largo pero es que esta es la dinámica de nuestros gobiernos

hay convocado y esto sí que es mi respuesta directa señor pastor un consejo de administración de lanbide para el próximo dieciocho de marzo para la semana que viene si toda la documentación está en orden y creo que lo estará porque debe estarlo

básicos del orden del día que son el punto décimo que es la convocatoria de ayudas económicas para la realización de acciones estratégicas formativas que se desarrollen por parte de las empresas de la comunidad autónoma del país vasco y el undécimo que es la convocatoria de ayudas económicas a la formación para el empleo de oferta dirigida prioritariamente a personas trabajadoras ocupadas si como he dicho se cumplen esos plazos previstos

pero por si tiene alguna duda las convocatorias del año dos mil doce

el ocho de mayo las convocatorias del dos mil trece ya con este gobierno el quince de mayo

pero al menos como usted puede observar en dos mil quince anticiparemos por lo menos un par de meses

no existe retraso por lo tanto en los trámites de gestión de las convocatorias y

por parte del gobierno del reino de españa del sistema de formación para el empleo del que estamos todos sobre aviso y el que queremos anticiparnos y

a la entrada en vigor de ese anteproyecto todavía eskerrik asko toña jauna pastor jauna zurea da hitza

bien le agradezco la información señor toña que despeja algunas de las dudas que teníamos sobre

y otras de voluntad política y como usted sabe en el dos mil dos

casi dieciséis millónes de excedentes de los fondos de formación que no habían sido gastados y se produce una reclamación

posteriormente pidiendo la devolución de ese dinero que a fecha de esta misma semana el lunes

indicando que ese excedente había sido entregado al gobierno vasco y por lo tanto el gobierno vasco podría haberlo devuelto perfectamente puesto que en su caja estaba no sucedió tal cosa el gobierno vasco miró para otro lado y dejó que hobetuz se peleara en solitario

el problema que existe ahora es que no se produjo efectivamente aquella devolución

mas de veinticinco millónes de euros en este momento no es una cifra baladí precisamente y por lo tanto mi pregunta concreta es cuál va a ser la postura que ustedes

que se celebra este lunes porque si no se da respuesta a la reclamación económica y a la resolución judicial

perfectamente y es lo que van a plantear los representantes del patronato por lo tanto si eso se produce ni convocatoria de cursos ni anticipo ni retraso hobetuz desaparecería directamente salvo que ustedes como gobierno que son

asuman el compromiso político y económico por supuesto de ejecutar la sentencia

y es una respuesta muy clara si ustedes van a tomar esa decisión u otra distinta porque en este casola resolución que se dé a este problema de carácter económico

sobre si se va a poder seguir manteniendo la fundación o los cursos de formación pasa a depender de lanbide o no se sabe que estructura con el peligro de que según la doctrina que inspira también la modificación legislativa estatal del partido popular

de servicios de formación es decir privatización del servicio por eso tengo mucho interés como grupo socialista

que conforman ese patronato junto con ustedes de saber cuál va a ser la respuesta que el gobierno va a dar a este tremendo problema económico

le agradezco sinceramente señor pastor que al menos el objeto de la interpelación haya quedado despejada y usted lo haya reconocido así

razonablemente por lo menos en la parte sustancial del mismo en cuanto a la convocatoria de hobetuz lo que usted plantea ahora es una cuestión diferente

novatoria que ha salido la semana pasada y sobre la que yo puedo decir lo que puedo decir porque como usted ha dicho el lunes

el competente para tomar decisiones en esta materia no voy a negar que el gobierno

tiene mucho que decir y si llega el caso

están bien controlados están ahí no nos los hemos podemos dar cuenta de ellos exquisitamente y si en el proceso que vaya a surgir con

supongo que el gobierno estará a la altura de las circunstancias y hará lo que tenga que hacer el gobierno no tienen ninguna intención de que hobetuz entre en preconcurso de acreedores fíjese si en eso se algo no tienen ninguna intención de que hobetuz deje de hacer lo que estaba bienhaciendo

se queden sin trabajo pero el gobierno en relación con esa cuestión plantea otra cuestión la planteará supongo en su día si es que hobetuz a su nivel en su relación con el sepe no es capaz de plantearlo en ese nivel entre hobetuz y

plantea una cuestión más trascendente las políticas activas de hobetuz

de empleo se cerraron todas estas cuentas y que nada había

porque se transfirió lo positivo y lo negativo los saldos deudores y los saldos acreedores

de momento vamos a esperar a la reunión de hobetuz vamos a esperar a cuáles son las posiciones tenemos posibilidad de presentar un incidente judicial en relación con esta disposición de devolver dieciséis millónes más nueve millónes de intereses recalculados porque al principio la

y después iremos tomando tiempo al tiempo las decisiones que correspondan las decisiones creo yo que hay que tomarlas a tiempo

hacerlo demasiado tarde también pero ahora vuelvo a la cuestión de la réplica porque me parece al menos para terminarla

pero la realidad como lo he dicho señor pastor es que no hay retrasos

en diferentes ámbitos de la formación continua en euskadi que respondieron a distintos objetivos y plazos ayudas económicas a la formación para el empleo de oferta

su desarrollo por parte de las empresas ayudas económicas para la realización de estudios y análisis y detección de necesidades de formación

y cualificación de los trabajadores ayudas económicas para la realización de acciones de apoyo y acompañamiento

estas convocatorias se materializaron en órdenes diferentes las fechas de resolución fueron posteriores

a su vez dos convocatorias de ayudas que dieron respuesta distinta a necesidades similares pero mejoradas de las que he citado del año dos mil doce luego los plazos

que dieron respuesta también a las necesidades y a las demandas de los agentes sociales y estas convocatorias fueron publicadas el treinta de julio del dos mil catorce la fecha de resolución de la convocatoria fue el diecinueve

de esas convocatorias los plazos para las mismas son del uno de enero del año de la convocatoria

le ofrece un tratamiento prioritario hay que reconocer las cosas como son adaptada a sus circunstancias la legislación nos dice además que las mujeres víctimas de maltrato pueden cobrar la rgi si solo cuentan con un año de padrón no se les exige

independiente pueden cobrar desde los dieciocho años pueden cobrar comunidad de convivencia especial durante dos años sin tener en cuenta los ingresos de los familiares

el problema es cómo verificar que la situación es real para eso

una mujer que dice que es víctima de maltrato la puedo creer pero no me basta con creer tengo que ver lo que dice la normativa y lo que me dice

mediante fotocopia de la resolución judicial pertinente o informe del ministerio fiscal que indique la existencia de indicios de que la denunciante es víctima de violencia de género en tanto

esto es lo que hacemos porque no tenemos otra manera de acreditar que una mujer es víctima de maltrato no impedimos no obstaculizamos a una

cómo lo vamos a hacer pero si tenemos que pedir alguna acreditación tenemos obligación por un estado de derecho razonable de exigirlo pero de buenas formas de buenas maneras

sino precisamente como la normativa lo tiene previsto acogiéndola más y mejor eskerrik asko

lanbide desde el primer momento pone en marcha un protocolo específico

para las víctimas de violencia de género son atendidas directamente por personas especializadas ya le digo pues no están tan especializadas pues lo que podemos

y esa estrecha colaboración permite tener en cuenta los informes realizados por los trabajadores y las trabajadoras
para conceder la rgi y a unidades de convivencia la dificultad es que estas mujeres eskerrik asko toña jauna

usted también es responsable la política de vivienda se ha nucleado en este gobierno alrededor de lo que se llama el plan director de vivienda dos mil trece dos mil dieciséis entre sus objetivos planteaba que en el programa bizigune para captación de vivienda vacía en el año dos mil trece se contara con cinco mil cuatrocientos

es decir quinientos doce viviendas menos que en el año dos mil doce y ochocientos sesenta menos de las previstas en este plan director el decreto cuatrocientos sesenta y seis barra dos mil trece redujo de seiscientos a cuatrocientos cincuenta euros

las retribuciones a los alquileres propietarios de las viviendas por lo cual

por la renta a percibir por lo tanto mientras se perdían seiscientos treinta y cuatro viviendas solo se captaron en ese periodo cincuenta y ocho viviendas quiero decirle que el gobierno socialista desde el dos mil nueve hasta el dos mil doce pasó

quinientos cincuenta y siete a cinco mil ciento dos es decir un incremento del doce por ciento los datos de estos objetivos del plan director que no se han alcanzado significan un diez por ciento menos de lo que había y un diecisiete por ciento menos de lo que se esperaba respecto del programa

porque de doscientos ochenta viviendas que se esperaban para el dos mil trece se terminaron con ciento cuarenta y cuatro

han elaborado una campaña que se llama abre tu casa cuyo coste es de ciento sesenta y cuatro mil quinientos setenta y cinco euros y que pretende captar cuatrocientos viviendas y a respuesta de pregunta formulada por el grupo parlamentario eh bildu el nueve de marzo

de finales de noviembre hasta ahora cincuenta y cuatro viviendas esta es una cifra muy baja que nos da a entender que en seis meses no se va a poder captar

de los objetivos de viviendas iniciadas para el alquiler que era fundamentalmente el elemento nuclear de ese plan director fomentar la política de alquiler se planteaba para el dos mil trece iniciar quinientos cincuenta solo se han iniciado setenta y nueve

por lo tanto señor consejero le pregunto en base a estos datos a estas evidencias cuál es el criterio del gobierno en relación a los programas de vivienda vacía e intermediación en el alquiler libre

somos rehenes de las estadísticas señor itxaso y yo no dudo que las suyas estén correctamente planteadas por lo tanto esta sea una pregunta difícil de responder por mi parte voy a responderle también con datos

vacías en nuestro país en el ocho coma siete por ciento del total del parque de viviendas de ellas el dos coma siete estaban consideradas como viviendas

por otro lado el régimen en alquiler se constituye como la opción más viable para muchos demandantes y además es

en enero de dos mil quince el setenta y tres por ciento de las personas demandantes del registro de etxebide demandaban una vivienda en este régimen de alquiler

un cambio de modelo en las políticas de vivienda priorizando las actuaciones de alquiler

caras para el presupuesto público que las de construcción de vivienda el quinto eje del plan director de vivienda establece acciones para disminuir el número de viviendas deshabitadas

en implantar políticas de vivienda en el marco de un modelo equilibrado y sostenible

a veces no siempre cumplan las expectativas el parque público de viviendas de alquiler hoy es de once mil cuatrocientos dos viviendas

hemos aumentado el parque de viviendas que es la demanda mayoritaria de nuestros ciudadanos hemos incrementado el número de viviendas propias del gobierno de cinco mil setecientos sesenta y siete

y estamos trabajando para captar el mayor número de viviendas vacías pero a un precio de alquiler razonable a través de la campaña abre tu casa ganas seguro

sé que no es suficiente pero es lo que

que facilita su gobierno y por lo tanto son evidencias que no maneja este grupo parlamentario por lo demás

con otros datos y otras estadísticas pero no me ha dicho cómo pretende revertir esta situación debo decirle que entre sus primeras manifestaciones cuando fue nombrado consejero una de ellas era la de que pensaba continuar la política de su predecesor y eso

efectivamente no hablan bien de la políticas de vivienda de su predecesor por lo tanto lo que le planteamos es

que ha entrado usted en un gobierno al que los focos en llamas de desatan por todos los departamentos mientras que el gobierno sigue tocando la lira

hagan algo más que ser un gobierno del powerpoint porque todo lo que sabemos hasta el momento es presentaciones diapositivas en fin todo este tipo de cosas pero lo que le pedimos es acción de gobierno concreta y real que

de la política del alquiler una realidad contrastable por las estadísticas y por los datos nada más y muchas gracias eskerrik asko itxaso jauna

he venido a un gobierno constituido me he integrado en él y creo que mi predecesor hizo lo que el plan de acción del gobierno

dentro de las restricciones presupuestarias a las que nos vemos sometidos siempre en estos tiempos de crisis

se modificó el programa de bizigune para posibilitar que las personas jurídicas pudieran ceder sus viviendas en stock algo hicimos en consecuencia en junio de dos mil catorce kutxabank cedió hasta cien viviendas que ya están siendo puestas en arrendamiento actualmente se están manteniendo contactos con laboral kutxa la caixa y la sareb para en el mismo sentido yo ya sé por experiencia propia cuáles son las dificultades de negociación con los bancos en estas materias de promociones inmobiliarias por otro lado en octubre de dos mil catorce se puso en funcionamiento

en este momento hay ochenta y nueve viviendas disponibles y se han suscrito noventa y cinco contratos

para difundir la existencia de estos programas en noviembre del dos mil catorce se puso en marcha una campaña que finalizará en junio de este año para informar

a los que quieran prestarnos sus pisos en alquiler además se están revisando las ayudas de rehabilitación

la propuesta para la exención del pago del impuesto de bienes e inmuebles vamos haciendo paso a paso lo que

ha causado mucha preocupación en buena parte de nuestra sociedad contemporánea

y desde luego enorme crítica profunda crítica en la comunidad científica el conocimiento del currículum de la religión católica recientemente

creo que el veinticuatro de febrero en el boletín oficial del estado y elaborada en su integridad

episcopal española en ese currículum se contiene elementos tales como será imposible conseguir la felicidad sin dios

más anticuada basada en el pecado original y en la salvación divina como única posibilidad o elementos tales como reconoce con asombro y se esfuerza en comprender el alumno el origen divino del cosmos que no proviene del caos y del azar usted señora consejera

es responsable garante en consecuencia

único espacio público organizado se hace al alumnado vasco por eso mi pregunta es teniendo en cuenta cuál es

cuál va a ser su actitud primero qué opinión tiene el gobierno vasco en relación a este currículum que es dogmático como nunca

y en segundo lugar qué va a hacer va el alumnado vasco

a ser evaluado sobre la cantidad y calidad de asombro que le produce el reconocimiento del origen divino del cosmos o por el contrario adoptará usted una actitud diferente de tal hecho

legebiltzarkideok egun on señora celaá comparto con usted que los conocimientos que se trasmiten a los alumnos a través de nuestro currículum

deben ser acordes a la verdad científica y le aseguro que así es

desde el punto de vista científico pero lo hace dentro del currículum propio de ciencias naturales como es lógico argi utzi nahi dut

sí señora uriarte yo ya sabía que usted iba a adoptar el camino fácil es decir

entre los estados y por lo tanto cúmplase déjese pero eso es inhibirse

es decir usted como gobierno e incluso nosotros como oposición ha de tomar camino en el dilema ha de tomar camino lejos de inhibirse

íntegra y en esa asunción de responsabilidad íntegra la suya se corresponde con que la oferta efectiva de conocimientos que lleguen al aula no sea contradictoria se imagina usted que de diez cero a once

estén aprendiendo comprendiendo a darwin

llegar a estar confundidos sobre el origen divino del cosmos usted tiene que comprometerse con esto tiene que empezar a hacer opinión la religión en la educación un asunto no resuelto y usted como consejera y yo como oposición tenemos que contribuir a la evolución de la conciencia social en este aspecto para procurar un acomodo razonable de la religión

sea fuera del horario escolar y en la escuela o sea fuera absolutamente de todo pero hemos de conocer su opinión usted no puede dejar que este asunto sea

ya tienen un acuerdo que se las compongan porque usted es una responsable política y

los teólogos y científicos llevan debatiendo sobre la acción divina en el mundo desde hace más de veinticinco años por cifrar una cantidad

que si les digo que me encantaría poder dialogar y debatir de manera distendida en relación a diversas teorías sobre la creación del universo me es igual la teoría del big bang la inflacionaria mil la mecánica cuántica o incluso la creacionista pero creo que no es ni momento ni lugar

en todo caso resulta curioso que usted nos pida explicaciones o soluciones dada la responsabilidad

además señora celaá que dichos acuerdos han estado vigentes durante todos estos años de los cuales veintidós gobernado por el partido socialista sin embargo ustedes nunca han hecho el mínimo esfuerzo de derogar o modificar dichos acuerdos y ahora que se abren nuevamente porque

el debate que ha estado latente desde mil novecientos setenta y nueve eskerrik asko uriarte andrea

consejera referente a medidas urgentes para evitar los repetidos fenómenos de desbordamiento en algunas cuencas fluviales de la comunidad autónoma vasca

de la señora consejera pero al tener conocimiento de que la señora consejera no tenía agenda disponible para esta comparecencia en un periodo razonable pues lo que nosotros presentamos ha sido esta interpelación decir que

y creo que tenía motivo que la petición de comparecencia hubiera sido presentada

y tal vez también de manera urgente porque yo creo que la situación lo requiere pero

y como todos ustedes saben una vez más el mes de febrero ha sembrado de angustia de impotencia de desolación

sus accesos y alterada de manera importante su actividad diaria

pero usted sabe señora consejera dónde se concentran los mayores problemas dentro de esas cien áreas y cuáles de estas requieren de actuaciones urgentes tenemos por ejemplo la cuenca del urumea que ya van a empezar las obras

martutene y podríamos decir que por fin se inician estas

pero la cuenca del urumea es más amplia por ejemplo si vamos

lamentaban las repetidas ocasiones en las que ven anegados

en sus palabras decían me da la impresión que esto no tiene pinta de mejorar en el futuro el rio seguirá desbordándose y nosotros los de siempre seguiremos pagando las consecuencias podemos trasladarnos a la cuenca del zadorra especialmente la zona que se encuentra aguas abajo de vitoria y

localidades como yurre como lopidana gobeo asteguieta estarrona subijana lermanda margarita mendoza trespuentes

cuyos habitantes están hartos hartos de sufrir inundaciones

cada vez que hay un periodo de lluvias intensas y que les hace soportar situaciones de corte de los accesos a sus viviendas daños en infraestructuras en fincas urbanas

los representantes de estos pueblos le han enviado señora consejera una carta el diecinueve de febrero donde le reiteran que las inundaciones se repiten sistemáticamente

cifras extraordinarias estas precipitaciones y le recuerdan

en la que se le solicitaban que se adopten todas las medidas posibles para recuperar la capacidad hidráulica del zadorra y

y se quejaban estos representantes señora consejera de no recibir respuestas por su parte señora consejera esto requiere una explicación porque no

ante una demanda lógica y sensata porque yo

intentando ponerme en la situación de estas zonas pues supuestamente estaría tan hartos como están ellos además el zadorra también se desborda

reiterados en zonas rusticas son muy importantes y se repiten sistemáticamente cuando llueve con intensidad elevada

ocasional ya se ha explicado en esta cámara

que para ura no representa ningún problema las fincas colindantes a los ríos

pero la señora consejera tiene que entender que el rió va perdiendo capacidad y que los desbordamientos cada vez son más importantes más reiterados y estos desbordamientos

fértil de las fincas lo que se suma a una perdida más importante y esto también es deterioro del medio ambiente y del sustrato que se da

suelos rústicos por lo tanto como le digo esto también supone daños importantes para el sector primario el mal estado de muchos ríos en nada contribuye a soportar situaciones de precipitaciones intensas y no digamos si como última ocasión han sido excepcionales y reiteradas hablaban en gipuzkoa de doscientos cincuenta litros tres veces más

medio de comunicación que yo vi realmente lo que vemos es que los daños han sido importantes

y yo le digo señora consejera cóomo es posible por ejemplo que en el rió zadorra en un punte en plena avenida se pudiera ver un remolque de un camión por ejemplo

con el gran riesgo que esto supone yo creo que esto también requiere de una explicación y como se mantiene el estado de nuestros ríos

señora consejera las necesidades y las demandas se acumulan hablamos de soluciones para evitar estas inundaciones que requieren inversión y yo sé que es difícil pero esto tiene que ser una apuesta del gobierno hablamos de situaciones que se alargan se prolongan y el hartazgo es cada vez mayor

una prioridad para el gobierno el planificar y priorizar las actuaciones necesarias para dar una solución a estas zonas del país vasco que ante periodos de intensas

se inundan sí o sí sabemos los puntos negros entonces yo lo que le

tienen una planificación en tiempo con presupuesto y periodo para poder afrontar

de que los afectados de alguna manera vean que hay un periodo de tiempo que van a soportar pero que hay una solución no podemos estar

y yo le entiendo su situación económica y la dificultad para llevar determinadas infraestructuras pero no podemos responder con paciencia a los ciudadanos tenemos que responder con una programación económica y en tiempo y en actuaciones

porque creo que ante eso lo que podemos es aunarnos todos en impulsar que eso llegue cuanto antes por lo tanto eso es lo que le preguntamos señora consejera

señora lópez de ocariz le agradezco su interpelación sobre este tema creo que es un tema de interés para todos y efectivamente a la hora de plantear

dado que entramos enseguida en periodo de semana santa etcétera se quedaba bastante retrasada en el calendario

de los que sufren reiteradamente este tipo de situaciones y desde aquí

del mes de febrero también aprovecho para decir que estamos trabajando en un decreto de ayudas que al igual que hicimos el año pasado

podamos por lo menos dar una salida a los daños producidos

en estos últimos episodios porque yo creo que podemos incorporar dos eusko jaurlaritzak aspalditik dihardu uholde arriskuaren mendeko hiriguneen babesean

que debe estar promulgado para diciembrede este año dos mil quince en cumplimiento de la directiva europea

relativa a la evolución y gestión de dicho riesgo tras cumplimentar en tiempo y en forma las dos

marcadas por la propia directiva como son la evaluación preliminar de riesgo de inundación en diciembre de dos mil once y la cartografía de peligrosidad y riesgo en diciembre de dos mil trece dicho plan actualmente está en información pública y contiene medidas de protección estructural de preparación y alerta ante avenidas y también de prevención

que imbrican la ordenación del territorio con la planificación hidrológica y la gestión del dominio público tendentes todas estas medidas a no reproducir en el futuro

mediante el respeto al fenómeno natural de las avenidas dentro del catálogo de medidas estructurales se incluyen naturalmente las que hoy están en ejecución como

y las que están siendo proyectadas para su ejecución lo más pronto posible como zalla en el cadagua laudio en nervión villabona zizurkil en el oria

independientemente de las medidas estructurales cabe destacar el sistema de alerta temprana que existe en la actualidad

y con una buena colaboración interinstitucional que quiero remarcar en este punto

se traslade a la población en general con un tiempo suficiente para poder minimizar los daños que se pueden generar en cuanto

solicitud de información de los afectados en la zona concreta de aguas debajo de los embalses de uribarri ganboa

ya hemos puesto una reunión creo recordar que es para la semana que viene si no me falla la memoria y trataremos con ellos todas estas cuestiones evidentemente

y algunos elementos que no entendemos cómo pueden estar

ante avenidas tan importantes y que pueden provocar

yo creo que pueden provocar riesgos importantes la herramienta que el gobierno tiene para la ejecución de las obras es la agencia vasca del agua ura que viene sus presupuestos a esta cámara y

presupuesto en inversión veinticuatro millónes seiscientos setenta y nueve mil para inundaciones tenía dieciocho millónes

más o menos y a mí me gustaría saber de estos dieciocho millónes

es decir en qué actuaciones se están dedicando porque usted ha aprobado ahora los diecinueve millónes para el encauzamiento de martutene ha aprobado veinticinco millónes de euros para el río gobela

en el río gobela o todavía quedan más cosas pendientes y bueno para álava desde luego no hay ninguna para inundaciones a no ser que estén dentro de estos dieciocho millónes

lo que me queda por saber yo creo que efectivamente los planes hidrológicos y toda la tramitación de obligado cumplimiento está ahí pero

de los riesgos de inundación aquí hay que programar

qué presupuesto vamos a poner en ura en los próximos diez años porque no creo que se pueda asumir todo lo que está pendiente en uno ni en dos ni en tres hay que hacer una programación no solo porque el gobierno en el caso que le corresponde

a disposición del gobierno para que haga determinadas actuaciones porque en esa coordinación hace falta una programación ya saber también

entonces yo creo que requiere de una planificación al margen y sabiendo ya que el plan hidrológico y los planes de gestión están casi elaborados ya sabemos qué obras hay que hacer entonces vamos a ver

si tenemos mayores ingresos en otros momentos pues igual se pueden afrontar otras pero saber qué es lo que podemos hacer y decir bueno aquí

es lo que el ciudadano afectado está esperando y tenemos la obligación de darle una respuesta por lo tanto

ustedes estarían dispuestos a hacer una programación con unas actuaciones aún periodo

de diez años cinco años no lo sé yo creo que eso también lo deben de considerar ustedes que sea didáctica al margen como no podía ser de otra manera en relación con los planes hidrológicos los planes de gestión pero algo que sea didáctico

en cinco años es posible que aquí haya una actuación porque mañana tenemos otra inundación y se va a repetir y otra vez nadie hace nada yo creo que también hay que explicar las dificultades que puede haber para determinadas actuaciones que los ciudadanos sepan y que en un periodo

se pueden realizar esas actuaciones eso es lo que realmente le queremos pedir

y una respuesta que sea por lo menos entendible a los ciudadanos pero que no tengan la respuesta de la paciencia

me entiende lo que le quiero decir una respuesta efectiva

un momento concreto con los vecinos del urumea porque efectivamente las obras empiezan ya

y tenemos que actuar pero en ese momento concreto y en ese contexto creo que no era tan desafortunada esa palabra bien

he querido distinguir en mi primera intervención un poco también lo que son

me he referido a todos los planes prevención etcétera porque creo que es muy importante con los pasivos que tenemos en nuestro territorio en este capítulo no incrementar los problemas por eso creo que la labor en prevención de inundaciones que hacemos desde las autorizaciones a los usos dentro de las zonas inundables

imprescindible y por eso siempre me gusta remarcarla a parte de eso evidentemente trabajamos en la resolución de esos pasivos

prácticamente los conocemos todos y están en las planificaciones están en las programaciones y además están metidos en los planes hidrológicos

la programación está en el capítulo concreto de las cuencas vertientes las cuencas mediterráneas

y ahí es donde aparece cuáles son prioritarias cuáles entran en el primer periodo de programación cuáles entran luego están todas esa planificación existe

tu casa o tus bienes o tus fincas agrícolas llenas de agua es muy difícil explicar nada pero desde luego le aseguro que lo intentamos no sé si lo conseguimos pero desde luego intentamos transmitir

una y otra vez cuáles son los problemas cuáles son los planes cuáles son las programaciones

en todas esas planificaciones hidrológicas que comentaba luego hay otro tercer capítulo que creo que también es muy importante resaltar

en la primera intervención las limpiezas se hacen de manera sistemática desde ura se establecen dentro de los recursos disponibles se establecen contratos de limpieza que todos los años se llevan a cabo en las cuencas de los ríos se establecen tres paquetes y se hacen

y se gestionan a través de las oficinas territoriales que tenemos en cada uno de los territorios suponen bastante dinero

en el caso de bizkaia fue un millón de euros prácticamente en gipuzkoa parecido

de limpiezas pero sabemos que no llegamos a todos y sabemos que no podemos abarcar todo el territorio y que los mejores agentes en el territorio y además

lo recoge el plan hidrológico son las administraciones locales son las administraciones locales ayuntamientos juntas administrativas

y por eso hemos establecido también o hemos puesto en marcha una iniciativa trabajo en colaboración con los entes locales que usted también me ha hecho una pregunta recientemente y le tengo que decir que hemos tenido una respuesta muy buena muy interesante por parte de muchos ayuntamientos de la comunidad autónoma que están dispuestos a firmar unos convenios con nosotros por los cuales de manera colaborativa iremos abarcando

más limpieza de los ríos pero además también hemos hecho la misma invitación a las juntas administrativas y también hemos recibido

no muchas pero creemos que es una línea de trabajo incipiente y que deberemos de ir

de cara a futuro también hemos recibido contestación de la cuadrilla de salvatierra o solicitud de la cuadrilla de salvatierra cuadrilla de aiara

a las que también nos gustaría atender y con los que estamos trabajando en esa línea de firmar convenios colaborativos a partir de ahí tenemos que establecer también qué son las limpiezas de los ríos evidentemente cuáles son los términos de limpieza cuando en un río tenemos

eso no es propio del río digamos esos son residuos sólidos urbanos es otra cosa y cuando tenemos un remolque

pero en cuanto a lo que se refiere a las limpiezas sistemáticas preventivas

lo hacemos de esta otra manera que son esas limpiezas sistemáticas y esperamos

sí efectivamente en el pleno

bata bestea igual paperak ere nahastu ditut efectivamente en el pleno de este

a que protegiéramos adecuadamente el ámbito definido en el documento del porn aprobado inicialmente para evitar las amenazas

de las actividades impactantes en general de los procesos de artificialización respetando y garantizando el desarrollo socioeconómico sostenible de los pueblos y potenciando su modo de vida forestal agrícola y ganadera

en aras de aunar el mayor consenso posible y sí señor

la protección y conservación activa de los valores de montes de vitoria queda

a formar parte de la red de espacios naturales protegidos de la comunidad autónoma objetivo perseguido por la orden del doce de febrero del dos mil diez que usted también conoce además la protección de los valores naturales que alberga la parte de áreas de montes de vitoria

está regulada y protegida por suficientes herramientas de planificación o instrumentos normativos que no solo permiten sino que también obligan a las administraciones a proteger y a conservar los valores naturales existentes no sé si usted ha leído

famoso yo sí no sé si usted lo ha debatido con las juntas administrativas con los ayuntamientos concernidos no solo el de vitoria

yo sí y mire le voy a decir ese porn aprobado inicialmente no prohíbe

aunque se tratara de actividades industriales que tuvieran relación con el aprovechamiento de los recursos naturales que existen en su ámbito actividades como la extracción de gas natural si lo hubiera solo podría ser objeto de prohibición por el porn cuando resultara incompatible con los valores ambientales que se protegen artículo diecinueve punto cuatro este mismo artículo establece además que en todo caso

en los supuestos que estas actividades puedan ser compatibles con los valores ambientales que se protegen

extractivas en espacios naturales se someterán a la preceptiva evaluación de impacto ambiental a cual incluirá los trabajos necesarios para la reposición de la situación anterior la recuperación de valores ambientales etcétera

que la directiva habitats que es de la que dependen las zec en lo referente a la evaluación de impacto ambiental obliga a realizar una adecuada evaluación del impacto ambiental

de cualquier plan o proyecto no solo de los que están dentro del ámbito sino de cualquiera de los que puedan afectar a los valores naturales del ámbito en cuestión

por supuesto que vamos a seguir protegiendo los valores y vamos a seguir los valores naturales de la zona de montes de vitoria
y por supuesto que vamos a seguir trabajando con las eskerrik asko oregi andrea